oyarzabal jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señorías señora consejera

aprobó ya en dos mil nueve por amplia mayoría además de este parlamento

la presencia vehicular de las dos lenguas oficiales de nuestras dos lenguas el euskera y el castellano

apostar así por un modelo trilingüe euskera inglés y castellano que nos permita avanzar en los próximos años con una política lingüística distinta en la educación se pidió además que esa apuesta garantizase el respeto a la libertad de elección lingüística de las familias

permitiendo que hubiese al menos dos modelos que se garantizase en todo caso que cualquiera de nuestras dos lenguas

lenguas vehiculares de la enseñanza por lo tanto nos encontramos ante un proyecto consensuadas en lo fundamental en esta cámara y que de alguna manera nos comprometía a todos la orden de dieciocho de mayo de dos mil diez convocó a los centros de enseñanza no universitaria como usted sabe a todos los sostenidos con fondos públicos

para el desarrollo de proyectos de experimentación del marco de educación trilingüe el primer año empezaron y participaron en ese proyecto en ese programa cuarenta centros escolares y en el curso dos mil once dos mil doce se incluyeron otros setenta y ocho centros educativos

en el año dos mil diez mil veinticinco profesores son los datos que tenemos manifestaron poseer alguna acreditación lingüística en inglés

seiscientos cincuenta profesores de la escuela pública y ochocientos veinticinco

también aportaron que ellos

de acreditar esa capacidad de dar clases en inglés se trataba de hacer una experimentación de tres años para elevar una propuesta definitiva

de la misma analizar lo que había pasado cuáles eran los problemas y cuáles las fortalezas el propio informe

para el sistema educativo leo detectar en el ámbito lingüístico aquellos aspectos que necesiten corrección y avanzar siempre en un clima

armonizando decía el derecho de los padres y madres a escoger la lengua de enseñanza de sus hijos con el objeto compartido de que el alumno logre al finalizar la etapa obligatoria una capacitación suficiente

situando como reto de nuestra comunidad la incorporación

la incorporación del inglés señorías y señora consejera como usted sabe es una prioridad para el partido popular el inglés su tratamiento en la escuela

es una prioridad para el grupo popular el tratamiento trilingüe en la enseñanza conecta a nuestro juicio directamente con lo que hoy es una demanda de las familias y yo creo que a la vista está también a la hora de analizar los datos de prematriculación y de matrícula de estos últimos años en dos mil diez

ya presentó ese plan de acción lo presentó ante la comisión de educación presentó un marco de acción con carácter experimental a él me he referido y se nos dijo en aquel momento

y una vez realizada la correspondiente evaluación se haría una propuesta definitiva

este planteamiento este plan este programa se hacía con un propósito claro y definido había que esperar exactamente al análisis

de ese proceso experimental para saber cuál debía ser el camino y el procedimiento concreto pero estaba claro que nos encontrábamos ante un proyecto y un propósito claro compartido y definido ese periodo es útil

definitiva se nos dijo en aquel momento por parte de la consejera se debían detectar en ese tiempo los problemas como decíamos antes las fortalezas las debilidades y sobre todo

a la capacitación de los profesores sobre todo aquí tenemos un reto la capacitación idiomática

ese es el gran reto que tenemos ante nosotros en este caso la capacitación en inglés de nuestro profesorado se pusieron en marcha

estancias semanales refuerzos en inglés becas

su aprendizaje personal auxiliar de conversación etcétera este señora consejera

un desafío el gran desafío de nuestro sistema educativo en los próximos tiempos o por lo menos

y creo que ese es un objetivo irrenunciable dentro de la política de su departamento pero el pnv y por eso hoy

cierto recelo hemos visto al pnv receloso con el inglés en este tiempo a pesar de que las necesidades contemporáneas de este mundo globalizado del conocimiento de la investigación y de la innovación cuya lengua franca es el inglés

más que nunca cada día más de esa apuesta pero yo tengo que recordar que la señora aurrekoetxea portavoz

de educación del grupo nacionalista en la anterior legislatura hoy forma parte de su gobierno de su equipo como viceconsejera

puso en duda aquellos programas criticó

verdaderamente muy escéptica en numerosas ocasiones con los resultados que íbamos a encontrarnos al término de esos tres años

interpeló en más de una ocasión al gobierno vasco

y es verdad que vimos siempre al pnv receloso con todo este programa y nos preocupa que además tratándose de una persona que forma parte de su equipo como viceconsejera

en los primeros pasos a usted tampoco le hemos visto tampoco muy explícita en la defensa en su opinión en relación con el trilingüismo sus primeros pasos sus primeras declaraciones no nos han aclarado nada sobre este asunto esperamos a conocer

atender su comparecencia en comisión y desde luego sus palabras nos producen todo lo contrario nos llenaron de incertidumbre porque usted ni siquiera pronunció la palabra

que tuvo de exposición de cuáles eran las líneas básicas de su programa por eso queremos que nos explique

nos diga qué es lo que quiere hacer ya sé que me va a decir

de curso eso es lo que me va a decir vamos a esperar a final de curso y a partir de ahí

además de analizar es lógico evaluar y a partir de los datos que conozcamos

una comparativa de lo que ha ido pasando hombre yo creo que hoy nos puede aportar algo más algo más que dejarnos a la espera yo creo que hoy nos puede decir

personalmente y su equipo apuestan realmente por el si esta es una apuesta del gobierno cuál es su opinión

quién se está ocupando de ello en su departamento la evaluación no se hace

ha habido ya procesos de evaluación

centros se han ido también observando deficiencias corrigiendo también problemas

nos gustaría saber exactamente qué esta haciendo cuáles son sus intenciones y sobre todo qué va a hacer qué va a poner de su parte

siga siendo una apuesta de nuestro sistema educativo nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andreak dauka hitza

considera que cualquier cambio en el sistema educativo tiene que tener como finalidad la igualdad de oportunidades para todo el alumnado así como la convivencia lingüística y la cohesión social consideramos que el proceso llevado a cabo estas décadas para euskaldunizar la enseñanza

ha sido muy positivo y ha contribuido eficazmente a la recuperación social del euskera se ha conseguido que sean precisamente las generaciones más jóvenes que han salido de nuestro sistema educativo las más bilingües igualmente creemos que la escuela puede contribuir en mayor medida a la consecución del conocimiento práctico de las lenguas oficiales en una palabra creemos que el sistema educativo puede contribuir aun más al bilingüismo ahondando precisamente en los resultados obtenidos hasta el momento que son francamente positivos

tendría que reformularse porque no contribuye suficientemente a la formación de una ciudadanía bilingüe ni a que el alumnado tenga un conocimiento práctico de las lenguas oficiales

porque además contamos con un profesorado preparado para atender a este nuevo reto y porque la superación del modelo a está prevista

la adquisición de la competencia lingüística no está ligada solo al modelo lingüístico

lo cual a su vez incidirá en la definición de los objetivos los objetivos planteados han de ser concretos realistas y alcanzables para la gran mayoría del alumnado contando en la actualidad con un modelo quinientos en crecimiento con un modelo b con tendencia a confluir

a decreciendo constantemente cualquier cambio debe ofrecer la seguridad de obtener unos resultados considerablemente mejores que los actuales por tanto

al conjunto del sistema educativo es absolutamente necesaria una fase de experimentación previa que asegure que los objetivos planteados son efectivamente alcanzables y que permita definir y preparar las condiciones idóneas

tal y como usted ha señalado en la interpelación la experimentación del marco de educación trilingüe

mediante una primera convocatoria en los centros escolares y este proceso se completó en el curso dos mil once dos mil doce a través de la resolución del dieciséis de mayo del dos mil once

tanto públicos como concertados y con representación de los tres modelos lingüísticos vienen experimentando un modelo trilingüe de acuerdo a los criterios y exigencias definidas en la citada orden

puesto en marcha por el anterior gobierno no es la primera experimentación porque de hecho

son centros que ya llevaban más de una década con experiencia plurilingüe como sabrá junto al proceso de asesoramiento

tanto de las tres competencias lingüísticas de euskera castellano e inglés como de dos competencias no lingüísticas matemáticas y ciencias en esta evaluación se vienen utilizando los estándares internacionales de pisa

este departamento de educación política lingüística y cultura consideró oportuno continuar con las acciones previstas para este curso

el compromiso adquirido con los centros integrados en este proceso de experimentación y por lo tanto con las familias de su alumnado así como la conveniencia de no paralizar las acciones ya puestas en marcha

durante este curso fueron entre otros argumentos de peso para tomar la decisión de continuar vamos a continuar con la evaluación de la experimentación o mejor dicho con la evaluación de los diversos proyectos lingüísticos presentados a las dos

así como la evaluación de otros proyectos plurilingües en marcha durante la última década

en relación con las materias elegidas para impartir en una lengua o en otra y en la medida de lo posible en relación con el nivel de competencia lingüística adquirido en cada lengua

tal y como lo adelanté en la exposición de nuestras líneas de gobierno aunque brevemente

es la búsqueda del acuerdo necesario para avanzar hacia el plurilingüismo desde un bilingüismo real y efectivo

y ello en un contexto en el que la libre opción de las familias ha llevado a una evolución en la que se siguen creciendo los modelos quinientos y b y el a

vamos a seguir trabajando por la igualdad de las oportunidades lingüísticas para el conjunto del alumnado conjugando los dos principios básicos del pacto escolar de mil novecientos noventa y dos que responden a la apuesta que se hizo por una sociedad bilingüe

y por otro la obligación del alumnado de adquirir un conocimiento práctico suficiente en ambas lenguas oficiales eta amaitzeko

muchas gracias señora presidenta señora consejera la verdad es que

es que usted viene con un discurso realmente que yo creo que está superado en esta cámara porque

de debates de los noventa casi de la década pasada al menos una discusión sobre la continuidad de los modelos en la que bueno podemos reabrir ese debate y yo seguramente creo que a la vista de su discurso necesariamente

a la batalla de los modelos pero creo que habíamos encontrado un camino para superar la vieja batalla de los modelos y encontrar un camino por el que transitar

no habla de trilingüismo no utiliza esa palabra insiste en hablar de bilingüismo los términos de la década anterior del bilingüismo pasa al multilingüismo y ni menciona la palabra

usted viene aquí a hablarnos de la superación del modelo a pasado mañana como todos sabemos ustedes estarán cuestionando el modelo b

que la solución en este transito

desde luego no supone ninguna apuesta supone un retroceso y más allá de la cantidad de infinitivos que ha utilizado usted al inicio de su intervención

etcétera yo creo que luego ha utilizado muchos hacer permitir cambiar ofertar claro es que para eso luego hay que

que se quiere y cuál es el problema cuáles son sus dudas habla de déficit ustedes no se creen

dicen que no se establecen los objetivos suficientes oiga se trataba de plantear un marco de acción a los centros abierto flexible no se trataba de imponer horas obligatorias se trataba de plantear tal y como le he dicho que decía

de que las lenguas estuviesen de manera suficiente presentes en nuestra escuela pero permitir que

pudiesen tener decisión sobre cuál tenía que ser el peso de cada una de las lenguas se hablaba de mínimos

y yo por eso le quiero preguntar dónde ve usted el problema porque está claro que desde luego ustedes no lo tienen entre sus prioridades el inglés no está entre las prioridades de este gobierno en la educación el inglés no está entre las prioridades del pnv y eso es muy importante

en este momento en el año dos mil trece este gobierno no cree que entre las prioridades del sistema educativo esté el inglés bien pero nosotros

queremos decirle que ese modelo trilingüe queremos defenderlo puede ser un modelo abierto y un modelo flexible

un mayor alto grado de consenso si no volveremos a la batalla de la década anterior y nosotros daremos una batalla desde luego que la vamos a dar pero creo que este permite a los padres elegir puede garantizar derechos y a la vez respeta la autonomía de los centros y desde luego muy al contrario de lo que usted dice

de ninguna manera puede suponer una desviación en los objetivos marcados en relación con los objetivos de capacitación de los alumnos al término de la etapa obligatoria en euskera

tiene que suponer un menoscabo en la consecución de esos objetivos todo lo contrario creemos que el inglés supone un desafío que además puede permitir reforzar todos los niveles de capacitación lingüística de los alumnos en los próximos años por eso nosotros le queremos insistir esta es una apuesta

del conjunto de la sociedad tiene que ser una apuesta del gobierno yo

a quién tiene trabajando usted en esto exactamente qué programas complementarios

que planteó la consejera celaá no le gusta nada qué va a hacer usted qué va a hacer usted para apoyar

cuál es su proyecto alternativo cuáles son los programas complementarios que usted haya

yo me temo mucho que creo que en este tema usted todavía
no tiene nada decidido y eso es lo que más nos llena de preocupación muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

nire posizionamendua hasta el momento se han completado dos procesos de evaluación

y una medición en los centros de la segunda convocatoria este curso

tendremos la oportunidad de llevar a cabo la evaluación final de los centros que entraron en experimentación en dos mil diez

por lo tanto las primeras medidas tomadas por este departamento en relación con las políticas de trilingüísmo

digo han sido por un lado un análisis inicial del proceso desarrollado y por otro tal y como

la continuidad de los compromisos adquiridos por la administración anterior pero sin duda

por ello en este momento tenemos y esto será de la mano de la viceconsejería de educación dos tareas sustanciales primero analizar con mayor profundidad la información disponible

y en segundo lugar concretar un plan de trabajo para el próximo curso que nos permita sacar mayor provecho a este proyecto no podemos tomar medidas sin tener realmente unos datos que nos constaten cuál ha sido el resultado de la prueba puesta en experimentación hasta ahora no podemos proponer ninguna medida sin saber a qué atenernos

tenemos que avanzar de forma inequívoca en la implantación de la enseñanza de una tercera lengua el inglés este gobierno apuesta por el inglés aunque no solamente por inglés también puede ser francés tenemos la frontera aquí al lado sin descartar la posibilidad de introducir la cuarta lengua

puede ser el alemán no tengo duda de que el gobierno apuesta por un modelo plurilingüe

cualquier actuación deberá contar además con un amplio consenso y apoyo que no creo que esto es lo que tuviera el programa anterior

de forma que se pueda recompletar la recogida de datos y resultados otra importante está relacionada con el

sobre los procesos y decisiones tomadas por los centros así mismo será necesario analizar en profundidad las necesidades formativas del profesorado

y su vinculación con el marco común europeo de referencia para las lenguas no basta decir que sé inglés hay que saber qué perfil de inglés se va a solicitar al profesorado

entonces para ello nuestra tarea es elaborar un plan de trabajo un programa de actuación para avanzar en la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado que deberá tener en cuenta los resultados de la evaluación y de otras experiencias plurilingües amaitzera nora eta laburbilduz

presidenta buenos días señora consejera la verdad es que a mí no me gusta cuando realizo una pregunta obligar

a responder con un sí o con un no quiero decir que

y quien debe responderme verá lo que libremente decide responder en todo caso sí que es cierto que esta pregunta es como para que se pueda

o con un no en todo caso espero que usted lo haga con un sí con un no o incluso con un no sé no contesto en todo caso yo voy a

pregunta y quiero recordar que nosotros llevamos tiempo pidiendo ayer mismo lo debatimos el necesario redimensionamiento de e i te be para adecuarla a los nuevos tiempos tanto a la situación de crisis económica como a la nueva realidad del sector audiovisual lo cierto es que sabemos que ha habido un pacto entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para elegir a la señora maite iturbe como directora general pero

sabemos el nombre pero no sabemos nada más y lo poco que sabemos lo cierto es que lo hemos conocido por la prensa por los medios de comunicación y lo que le hemos podido leer a la señora iturbe ha sido básicamente lo siguiente que mantendrá

del ente que descarta el cierre de centros de producción y que cambiará el mapa del tiempo digamos que esto es lo más importante que tenía que decir la directora general de e i te be en estas primeras semanas

reflexión que también quería realizarle se han producido drásticos recortes presupuestarios en e i te be

en los últimos años y lo cierto es que a pesar de ello en fin nosotros no hemos visto protestas ciudadanas por este hecho hemos visto protestas ciudadanas por los desahucios hemos visto protestas ciudadanas por los recortes en sanidad por los recortes en educación pero lo cierto es que este recorte presupuestario

para el conjunto de la sociedad lo cual nos da la razón cuando nosotros proponíamos

cosas como ciento sesenta ciento setenta millónes de euros de dinero público

en todo caso nosotros queremos saber el modelo que ustedes defienden para

clara y directa puede usted garantizar el mantenimiento del empleo en e i te be muchas gracias señora consejera

señor maneiro a su pregunta si puedo garantizar el mantenimiento de empleo del grupo e i te be

garantiza la plantilla del ente si bien será el propio ente dentro de su autonomía organizativa quien deberá priorizar el destino de dichas cuantías a las necesidades que prevea

sí gracias señora consejera lo cierto es que esperábamos una respuesta tan breve como la que usted ha dado

la plantilla en el ente y seguimos sin saber nada de cuál es el modelo que se defiende para e i te be da la sensación de que aquí nadie sabe qué es lo que va a pasar con e i te be y qué decisiones se van a tomar y si se van a dar los pasos para redimensionar el ente yo únicamente quiero decirle que estamos en una época de recortes drásticos de recortes sociales y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta también para el futuro de e i te be y por lo tanto nosotros veremos en las próximas semanas qué es lo que va ocurriendo qué decisiones se van tomando

ya hemos pedido la comparecencia de la directora general la señora maite

lo que digo qué modelo defiende qué es lo que quiere

el futuro de la plantilla que es lo que va a ocurrir y el futuro de la televisión pública vasca nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

sustatu eta bermatu behar dugu como usted ha dicho

bueno dice no lleva apenas una semana la señora maite iturbe como directora del ente y esperamos que en unas

pueda traer aquí sus líneas estratégicas y poder contarlas eitb komunikazio taldea gure gizartearentzat erakunde guztiz estrategikoa da

en relación con su pregunta el día trece de febrero como usted ha manifestado los servicios de seguridad

con relación al protocolo de eliminación de carteles pintadas y pancartas comunicaron al ayuntamiento de bilbao la existencia de una pintada en el ramal de olabeaga detallando que se trataba de un mural a ras de suelo de dos por cinco metros de dimensión con la leyenda yolanda gogoan y la estrella de segi justo en estos términos y quiero destacar esto y sin más especificaciones esta comunicación se

porque creo que es necesario contextualizar cuándo se produjo y dos días más tarde efectivamente siguiendo el mismo protocolo de eliminación de carteles pintadas y pancartas la ertzaintza recibió una respuesta del ayuntamiento de bilbao

había sido cubierto con una capa de pintura blanca entiendo que el hecho de no haber recogido en su integridad el texto pudo provocar que tampoco se hiciera una interpretación más detallada de su significado y por tanto condujera a esta acción

ondo ezagutzen dugu la consejera de seguridad dijo en esta sala no hace mucho y no con demasiado convencimiento que reconocía el dolor

al debate que se dio sobre la formación que emilio hellín moro

cuerpos policiales entre ellos la propia ertzaintza queremos saber en qué términos y por qué

memoria justicia y reparación no sabemos cómo

la interpretación de este mensaje cómo realizó esta decisión de su borrado si conocen algo de la historia reciente de este país o si sabían que yolanda gonzález estaba reconocida por la oficina de víctimas del terrorismo

andrea efectivamente le he comentado ya en un primer momento que seguramente el hecho de que el texto recogido por

es decir limitándose exclusivamente a esa información pudo ser motivo de que la interpretación no fuera justa a mí no me duele en prendas en reconocer que se cometió un error que se pudo cometer un error de interpretación

de la cantidad de espacios públicos que han venido llenándose por

sino que era la estrella que correspondía al partido

que estamos revisando los protocolos de actuación como tampoco me duele en prendas en reconocer que esa sensibilidad que usted

echarnos a faltar desde luego no es una etiqueta que usted pueda repartir

voluntad a diestro y siniestro por tanto decirle que la sensibilidad hacia las actuaciones que tenemos unos y otros desde luego

aspecto creo que usted menos que nadie puede dar lecciones de esa sensibilidad y no me estoy refiriendo exclusivamente a este caso del mural del ramal de olabeaga con todo esto

el mural ha vuelto a ser pintado y el mural sigue en ese espacio reconozco este error e insisto que las referencias que pudo hacerse en ese informe

lo hemos reconocido y así hemos actuado eskerrik asko

buenos días señor consejero lo cierto es que el departamento de salud parece querer abandonar o quizás ya mejor dicho

llamado a ser el mayor del país vasco y uno de los más punteros de españa

lo ha hecho cuando el proyecto se hallaba en una fase muy avanzada de licitación y para el que el anterior gobierno autónomo

muy favorables que ahora habrá que devolver con la correspondiente indemnización y ayudas comunitarias a fondo perdido que jamás se llegaran a ingresar lo cierto es que

consternada y los representantes políticos que somos sensibles a la comunidad investigadora también lo estamos estamos consternados francamente sorprendidos creemos que tal decisión supondrá un freno a su labor y echará por tierra la reputación vasca en lo que se refiere a materia científica

el departamento de salud paraliza la construcción del edificio que estaría dotado de tecnología puntera

y desde luego no es la mejor manera de defender la marca euskadi en su lugar el departamento de salud se ha comprometido a habilitar dentro del propio hospital de cruces un espacio para los setenta grupos de trabajo adscritos a biocruces para liberar este

las autoridades sanitarias cuentan con el traslado de los laboratorios al nuevo edificio adscrito al hospital universitario que se inaugurará próximamente esta

y porque estarían dispersas al fin y al cabo uno de los objetivos del proyecto biocruces erá integrar a todos los grupos de investigación que funcionan vinculados al hospital

y dar de ese modo coherencia científica a su trabajo tal decisión podría suponer no lograr la certificación como centro de excelencia para biocruces

para mantener la actividad investigadora la sorprendente decisión del gobierno vasco de paralizar

solicitado por el anterior consejero de sanidad señor bengoa lo que podría tener un coste de alrededor de medio millón de euros además

de hasta diez millónes de euros esta decisión supone un mazazo

en materia de investigación biomédica un freno a la llegada de científicos y un aliciente para que los investigadores que trabajan aquí se nos marchen

un mazazo a la marca euskadi en fin por todo ello le interpelamos señor consejero sobre
de este proyecto que nosotros consideramos absolutamente imprescindible nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

behintzat tenga usted seguro que no le vamos a dar un mazazo a la investigación ni a la sanitaria ni a la no sanitaria nos interesa enormemente la marca euskadi nos interesa enormemente

de forma decidida la continuidad del instituto biocruces yo creo que debería todo el mundo intentar hacer la reflexión de que una cosa es la investigación otra es el apoyo a la investigación

de oportunidad de construcción de un edificio que va financiado con un crédito como el que yo tengo en mi casa va usted al banco y pide un crédito entonces se lo financian eso no es que tiene la financiación garantizada eso es que habrá que pagar es un crédito

no se ha inventado el año pasado ni el anterior ni el anterior del anterior lleva años y los sucesivos gobiernos han invertido en momentos de mayor bonanza económica

e importantes apoyos a los investigadores y esto es una obviedad para todos ustedes porque lo conocen desde hace tiempo todos sabemos también

adecuada mejorable sin ninguna duda pero adecuada y que la investigación del hospital universitario de cruces no puede depender ni nunca ha dependido de un único edificio de un edificio que tan solo retrasamos y que probablemente en ningún caso hubiera estado finalizado para el año dos mil quince como se planteaba en el proyecto teniendo esto en cuenta y analizando la manera de garantizar la sostenibilidad del proyecto nos ratificamos

a la disponibilidad de recursos suficiente y razonable dentro del contexto sanitario vasco el departamento de salud como planteé en la comisión

estamos en este momento estudiando la reordenación de los centros y estructuras de apoyo a la investigación e innovación en el ámbito sanitario vasco se pretende especialmente

para optimizar costes y mejorar su rendimiento global aprovechando el conocimiento sobre la materia acumulada estos años la financiación existente

y a otras medidas que permitan al centro reunir los criterios de calidad exigidos por el proceso de acreditación

necesarios en el plan de inversiones del departamento de salud para el año dos mil trece aconsejan retrasar la construcción del nuevo edificio

y de forma reiterada hemos mantenido en consecuencia el departamento de salud y la dirección del hospital están ya trabajando para adecuar las instalaciones existentes para albergar el instituto también estamos valorando

así como la reasignación de los fondos feder disponibles

de austeridad y reducción de estructura en los organismos y entidades del sector público el departamento de salud

es el más idóneo lo vuelvo a repetir el modelo de investigación que promueve el instituto carlos tercero nos parece el más idóneo para procurar un desarrollo sostenible

investigación en los hospitales pegada a la cabecera del enfermo

del proyecto del instituto biocruces de este modelo hacia otras latitudes científicas

se corresponde más bien con otro tipo de centros de investigación la investigación traslacional

a la cabecera del enfermo y que es la propia de los institutos sanitarios de los hospitales está fundamentada en el extremo clínico

básico el extremos básico del binomio corresponde al ámbito

solo aquella investigación básica orientada a la resolución de problemas de salud

a la investigación clínica tenemos una apuesta decidida

a pesar de la actual coyuntura económica y creemos que no se va haber amenazado por el retraso del proyecto de construcción de un edificio

ya estaba prevista y destinada parte a laboratorios de investigación además la adecuación que se ha hecho de nuevos despachos para los equipos del instituto

en el edificio de servicios generales solo falta añadir

que ha sufrido recientemente problemas por el acondicionamiento de su ventilación si tenemos en cuenta que para la acreditación por el instituto carlos tercero piden dos mil metros cuadrado dedicados a la investigación en el recinto hospitalario

pero el instituto biocruces actualmente y yo no lo he modificado dice en su página web que dispone

que serían válidos para la acreditación se puede concluir que ahora mismo tiene ya el doble de espacio de lo que necesitaría para la acreditación luego el edificio

el éxito del proceso de acreditación y esperamos que lo tenga va a depender de la calidad de la investigación científica del hospital lo que se traduce en el número de proyectos de investigación que hayan conseguido obtener financiación pública competitiva

y otros productos ninguna de estas actividades se improvisan en unos meses

sino que son fruto de la trayectoria del hospital de cruces y del esfuerzo investigador desarrollado por su personal al menos durante los últimos seis ocho años cuando menos

por otra parte la acreditación proporcionará solo una parte de los fondos

y solo si el centro es suficientemente competitivo los conseguirá

esa ayuda será bienvenida y junto con las sinergias que se fomentarán con las demás estructuras

confiamos en su sostenibilidad que no en su autofinanciación en cuanto a las ayudas económicas solicitadas el proyecto original del edificio tenía un coste de catorce millónes de euros

dinamización del sistema nacional de salud contemplaba la concesión de un crédito por el setenta y cinco por ciento de ese coste así se obtuvieron

sin embargo la licitación de obra como he repetido en mi primera intervención no se realizó hasta veintiséis meses después

a la vista de las nuevas dimensiones adquiridas por el proyecto y el incremento del coste del mismo hasta alcanzar veintidós millónes de euros la licitación

de forma parcial y para la primera etapa de la construcción no se licitó dinero suficiente para construir ese edificio el presupuesto para inversiones del gobierno

contabilizaría en el conjunto de inversiones para el dos mil trece del departamento de salud

este edificio que no el proyecto de biocruces que no está fuera de los planteamientos del departamento de salud el retraso en la ejecución del edificio podría implicar una prórroga de ejecución de la entidad pública que concedió el crédito lo cual es factible

pero también existe la posibilidad de que devolvamos el crédito hasta tener certeza de las previsiones presupuestarias de los próximos años

una segunda ayuda solicitada fue la de fondos feder a mediados del dos mil doce se trata de fondos europeos

pero estos fondos no los va a perder la comunidad porque la capacidad del país vasco es superior a la que le corresponde

de este gobierno en la comunidad autónoma eskerrik asko darpón jauna denbora amaitu da

nosotros creemos que es una mala decisión señor consejero en fin otra vez la excusa de la situación económica en la que nos encontramos

otra vez la excusa de los ajustes como primera razón o razón fundamental para abandonar este proyecto porque efectivamente sí que se abandona en nuestra opinión

por delante la excusa de los ajustes y de la situación

hizo o hicieron anteriores gobiernos más allá de lo que hizo el señor

aquí o allá o más allá de lo que debió hacer el señor lópez y efectivamente no hizo más allá en definitiva de repartir culpas

realizada al actual gobierno y al actual consejero

en respuesta a esta interpelación lo que ustedes vienen a decir es que este proyecto puede esperar que es una forma en nuestra opinión de abandonarlo y de perder en nuestra opinión las ventajas o las ventajosas condiciones de financiación que llevan consigo y nosotros décimos que esto no puede esperar

algunos grupos políticos los que estamos consternados ante esta decisión si no que son los propios investigadores los que están consternados y no comparten en absoluto

efectivamente otros proyectos sí pueden esperar otros proyectos innecesarios socialmente innecesarios otros proyectos

sí pueden esperar pero esto nosotros consideramos que es un proyecto absolutamente estratégico y consideramos que este edificio es absolutamente fundamental para que tenga viabilidad y que tenga futuro y por lo tanto nosotros presentaremos la correspondiente interpelación para que el gobierno mantenga mantenga el futuro de este edificio y por lo tanto de este instituto

señor consejero miembros del gobierno en esto es en lo que no hay que recortar en esto es en lo que no hay que ajustar

o eliminar gasto superfluo hay que eliminar partidas identitarias hay que abandonar definitivamente proyectos faraónicos hay que abandonar definitivamente proyectos que en los últimos tiempos se han planteado y que no tienen

en nuestra opinión es un proyecto estratégico hay que proteger y garantizar la investigación y hay que proteger y garantizar la investigación biosanitaria

pensamos que hay que defender a los investigadores no poner frenos a su llegada y desde luego evitar que se vayan y este proyecto y este edificio en nuestra opinión imprescindibles vamos a perder una financiación ventajosa cuantifique por favor usted el coste de frenar biocruces cuantifique cuánto nos costaría en todo caso ya digo nosotros presentaremos la correspondiente interpelación

al gobierno vasco que continúe con el proyecto del instituto biocruces y con este edificio para que sea realidad cuanto antes

es bastante lógica y bastante clara en cualquier caso me ha contestado

hablando de otra cosa de las obras faraónicas parece que hay determinadas frases que vale lo mismo para un roto que para un descosido en la primera parte de mi intervención creo que he expuesto de forma clara

y también he intentado explicar que hay que diferenciar claramente de lo que es

proyecto edificio el proyecto biocruces va a ser nítidamente apoyado el edificio

de nuevo para que no me diga que la decisión es estrictamente económica por qué pensamos que la estructura del instituto no es

la dimensión adquirida es su estructura de gestión pregunte usted a los investigadores no se parece en nada de estructuras de otros institutos de investigación exitosos de esta comunidad y de este departamento como por ejemplo biodonostia la dimensión del nuevo edificio planteado

se parece más a el corte inglés de bilbao que a cualquier otro edificio de investigación

durante la última etapa de su planificación no ha recibido un marco

por estas razones nos parece que lo que tenemos que hacer es evaluar el proyecto y lo vamos a evaluar y lo vamos a apoyar

saber a qué dedicamos el dinero del contribuyente es para lo que nos han elegido y en este caso usted le pregunta a los investigadores pero yo le voy a preguntar a la población de urduliz a la población

a la población de los centros de salud de gasteiz a la población del centro de salud de portugalete porque creo que hemos intentado dejar claro que

es el que es pero le vuelvo a repetir no es solo

el edificio lo que hace que queramos evaluar el proyecto en su conjunto en este momento nos parece muy importante recuperar la integración del instituto en el hospital y en el sistema sanitario público vasco

adecuar sus objetivos científicos a las necesidades clínicas del sistema sanitario público vasco

en un hospital no tiene que ser investigación básica

integrar las infraestructuras y las necesidades de equipamiento en los servicios

el sistema de ciencia y tecnología de euskadi y procurar la sostenibilidad

del instituto optimizando todos los recursos disponibles dentro y fuera de la sanidad vasca eskerrik asko eskerrik asko

zurea da hitza eskerrik asko mahai buru andrea señor consejero iniciamos una nueva interpelación permítame

son momentos de invertir en las personas y así vamos a centrar el esfuerzo en las inversiones de carácter social en equipamientos vinculados a la sanidad y a los servicios sociales ya vemos cómo sigue los socialistas suscribimos al cien por ciento estas palabras

en su discurso de investidura hace apenas tres meses y ese compromiso que adquirió para tener el respaldo de la cámara para ser lehendakari ya está roto

con una idea sencilla y con el mismo ánimo que emplean los budistas

esta va a ser la legislatura de las personas no del ladrillo vamos a gastar en personas no en ladrillo y esta idea a parte de ser una autoenmienda a la totalidad en todo regla con respecto a lo que dijeron hace tres meses se asume con gran facilidad porque no escucha

a los ciudadanos usted qué prefiere que recorten prestaciones sanitarias o que recorten construir hospitales seguro que todo el mundo diría prefiero que se recorte construir hospitales pero eso es una pregunta falsa

a un gobierno le corresponde ofrecer soluciones el ejecutivo anterior así lo planteó cuando los socialistas accedimos al departamento de sanidad lo hicimos con una pregunta previa en qué nos gastamos los impuestos que los ciudadanos dejan en nuestras manos y que se destinan a proteger su salud

pero que el servicio la organización y las infraestructuras el denostado ladrillo para usted estaba pensado en atender enfermo agudos

en la que trabajan miles de profesionales y que está destinada a atender a más de millónes de personas una gran tarea que evidentemente no es para una sola legislatura

en esa estrategia se incluían todos los aspectos sanitarios también las infraestructuras eso que usted llama despectivamente ladrillo que es

donde se le rehabilita donde se le ingresa para ser tratado de sus enfermedades y así

también en infraestructuras y se valoraron las carencias de este sistema que atendía cada año

un sistema que estaba llamado a seguir atendiendo a una población que vive más años

en esa planificación como usted sabe hubo sus más y sus menos

y desde la ciudad se pedía construir un tercer hospital algo inasumible en ese momento y que permitía soluciones mejores

como usted conoce aquella propuesta se dimensionó de forma adecuada

su potencial de extensión y las posibilidades actuales y con todo ello se hizo una planificación se proyectó unificar los dos hospitales de agudos existentes en vitoria

un hospital para enfermos sub agudos la gran laguna sanitaria de la ciudad porque la única infraestructura para esta prestación el único ladrillo para los crónicos para una población de más de trescientos mil personas

genera múltiples trastornos y rechazos de pacientes y sus familias y en algunos casos la imposibilidad de recibir el propio tratamiento

no se van a desplazar a leza diariamente para hacer la rehabilitación

pues bien esta carencia de acuerdo a esta planificación quedaba resuelta con este hospital de sub agudos previsto dentro del proyecto universitario de álava y la reordenación de los servicios usted señor consejero en comparecencia ante la comisión parlamentaria de salud sí bien reconoció la necesidad

también señaló que no iba a ser su prioridad la oferta de esta infraestructura el ladrillo argumentó siguiendo el mantra pero a nosotros

sobre todo porque no responde a un criterio a una planificación no tiene en cuenta el aumento de pacientes que demandas servicios públicos sanitarios y la atención que se les debe prestar eso se hace previendo

y esto no se hace en un intercambio de cromos por necesidades de partido esto no se hace en un te prometo esto si me das esto otro hablamos de salud hablamos de un

que no es un lema es una exigencia para quienes creemos en la igualdad de oportunidades hablamos de que cualquier persona con independencia de su origen idioma raza religión y también con independencia de su disponibilidad económica tenga derecho a ser atendido con los mismos recursos y cuando lo necesite

hay quienes sí saben donde se crean necesidades sanitarias a medio plazo y están invirtiendo en ladrillo están haciendo hospitales

y cuando por no invertir en hospitales públicos se aparezca las necesidades habrá que acudir a los privados o sea o bien paga uno de su bolsillo el nuevo hospital

y la oferta de un hospital de crónicos o sino con el dinero de todos los impuestos

privados para atender los rotos que tenga la sanidad pública a nosotros nos parece muy bien que exista la sanidad privada nos puede parecer muy bien que haya servicios a los que acceda la gente que desee pagar por ellos pero

de ninguna manera puede ser el plan b de la sanidad pública el plan b de la sanidad pública sigue siendo la sanidad pública por ello queremos saber

en cuanto a la oferta de hospital de crónicos para vitoria eskerrik asko roncal andrea erantzuteko txandan

empezaré por la contrarréplica y lo diré alto y claro este gobierno este departamento de salud y este consejero en el tiempo en el que esté va a apostar nítidamente por un sistema sanitario público y de calidad además estoy seguro de que usted no tiene ninguna duda al respecto

creo que en infraestructuras y cualquiera que conozca osakidetza se ha invertido bastante durante mucho tiempo

es una de nuestras fortalezas seguramente esto que le estoy diciendo no podrán decir otras comunidades y además fortalezas en infraestructuras sanitarias

públicas por lo tanto nosotros sí nos creemos que esta es la legislatura de las personas sí yo no soy despectivo con la construcción pero esta

nos coincide muy bien tenemos buenas infraestructuras

y vamos a apostar por las personas y por los profesionales en la comparecencia inicial del departamento de salud

durante los próximos años una de ellas desarrollaba la atención específica que requieren la cronicidad la vejez y la dependencia el actual envejecimiento en nuestra población y que proseguirá en el futuro sitúa a estas personas

desde nuestros servicios sanitarios conjuntamente con los servicios sociales para ello

hemos decidido progresar en el despliegue de una estrategia de integración asistencial entre la atención primaria y la atención hospitalaria nuestro objetivo es dar coherencia y buscar sinergias entre los dos niveles del sistema sanitario

sean menos fragmentados más coordinados más eficientes en definitiva de mayor calidad lo que entendemos que necesitan los pacientes crónicos los pacientes mayores y los pacientes dependientes sabemos que no tenemos una fórmula inequívoca de éxito para conseguirlo y que las circunstancias locales y las características de los sistemas de salud condicionan a la práctica

nuestra propuesta pasa por la agrupación de los centros de atención primaria con su hospital de referencia en demarcaciones geográficas definidas de la

serán responsables en las llamadas organizaciones sanitarias integradas el desarrollo de este proyecto supondrá cambios en la fórmula de gobierno de las organizaciones

a trabajo conjunto y cambios en la integración de servicios clínicos en los procesos asistenciales

una de las características principales de este modelo es que serán los profesionales de atención primaria quienes protagonicen el control del paciente crónico anciano

y el personal de enfermería de atención primaria deben ser los gestores y los responsables de estos pacientes y de su proceso asistencial manteniendo y tratando al paciente

la atención hospitalaria debe quedar como referente para patologías más complejas

y debe también potenciarse su papel de consultor del médico de atención primaria asimismo

el sistema sanitario debe trabajar coordinadamente con las áreas de bienestar social de las distintas

es indispensable en los últimos años hemos avanzado pero actualmente necesitamos abrir una nueva etapa de mayor colaboración

coordinar mejor nuestra interdependencia en la prestación de un servicio integrado y decalidad en base a este marco previamente definido voy a centrar señora roncal las atenciones o las acciones a llevar a cabo en álava en relación a los pacientes crónicos

y antes de empezar sí le voy a decir brevemente que nosotros no creemos que hay que dejar el hospital de santiago apostol para pacientes crónicos no lo creemos

permítame decírselo en álava para este tipo de pacientes contamos con una excelente red de atención primaria de salud mental

el hospital de leza dispone de unas instalaciones recientemente rehabilitadas e idóneas para atender a este tipo de pacientes sin embargo y lo planteamos en la comisión

de que su accesibilidad para los ciudadanos de vitoria gasteiz en términos de distancia supone una dificultad para pacientes y sobre todo para familiares y acompañantes pero permítame yo me lo he encontrado así no lo he visto solucionado en el periodo anterior

sigue siendo la misma y no ha quedado en vitoria gasteiz

ni concertado ningún centro de subagudos ha creado un proyecto poco compartido

ni entre organizaciones sindicales ni entre los trabajadores ni entre los ciudadanos ni entre los grupos políticos estamos actualmente estudiando las necesidades sanitarias que pudieran ser susceptibles de este recurso para mejorar la atención y lo vamos a hacer conjuntamente

y la organización del hospital universitario de araba así de cara a un futuro inmediato nuestra intención es articular alternativas

porque la vemos tiene usted razón hay una necesidad

resuelve con dificultad en esta línea contemplamos tres posibilidades la primera pasa como es lógico la optimización del hospital de leza sobre todo para dar servicio a rioja alavesa y también como complemento del hospital universitario

demasiado próxima a la realidad actual y por lo tanto no nos va a parecer la más adecuada en segundo lugar

sobre la posibilidad de disponer de un determinado número de camas específicas destinadas a atender a personas con necesidades propias de la cronicidad en una o en las dos sedes del hospital universitario de araba actualmente estamos trabajando en la definición de la tipología de los pacientes en su cuantificación

y en la coordinación indispensable con el resto de recursos especialmente con la atención primaria y con los servicios sociales estas camas

respondiendo a un modelo de atención enfocado al paciente crónico esta experiencia que tampoco es nueva existe en el hospital donostia existe

la tercera posibilidad que también estudiaremos en virtud del volumen de demanda y del ritmo de desarrollo de estas unidades es concertar algunas camas de estas características en alguno de los centros sanitarios de vitoria gasteiz probablemente

la solución pasa por una combinación de las tres primeras alternativas o de las tres alternativas

consistirá en la creación de una estructura específica para hospital

en la ciudad de vitoria gasteiz eskerrik asko darpón jauna

señor consejero como habla de integración

y nos pone por ejemplo el de donosti que es un centro exclusivo

el centro que antiguamente se llamaba hospital de amara me quiere usted decir que va a hacer lo mismo con basurto y con cruces por qué no cierra santa marina entonces oiga si ese es el modelo

en basurto en cruces en galdakao y en todos los comarcales de gipuzkoa si ese es el modelo pero si el modelo es utilizar un recurso específico para crónicos que tiene unos costes como usted sabe infinitamente inferiores al de los hospitales de agudos entonces

y esto que usted nos pone aquí una mezcla de

y camas en las dos sedes ya le digo tan absurdo como poner camas en basurto

para atender enfermedades muchísimo más complejas y con instalaciones muchísimo más caras y complejas que para atender enfermedades de

pero claro le queda la tercera solución la que usted nos dijo en el día de la comparecencia concertar

fíjese usted el presupuesto más social de la historia de euskadi

pero bajan todas las partidas menos una cuál oh sorpresa la concertación qué curioso señor consejero

parar para transferir a otros los recursos nada de avanzar llámelo usted ralentizar aplazar o posponer todo es parar usted ha recibido en herencia

reconduciéndose hacia la nueva realidad tanto actual como futura y lo que usted va a dejar en herencia es un enorme cartel de stop stop a cruces

stop al hospital de eibar stop a las consultas externas de zumarraga

stop al necesario aparcamiento en mondragón para poder

stop stop a todo y nos habla de derivaciones que antes no se daban

con dudosas explicaciones que justifican lo que en la práctica es la supresión de un servicio público para transferirlo al privado somos conscientes de las dificultades económicas

yo no sé si es así pero sí sé que en el primer año del gobierno socialista faltaron dos mil millónes de euros porque había un presupuesto

y a gastos y se tuvieron que establecer prioridades y planificaciones

en el ámbito sanitario se mantuvo la atención existente y se diseñó el escenario para los años siguientes los de esa legislatura y los de la siguiente

lo que le pedimos es un proyecto una planificación razonada y yo no le he hablado siquiera de dónde tenía usted que poner el hospital de crónicos se ha puesto usted la venda antes de la herida díganos usted dónde quiere poner ese equipamiento tan necesario para la ciudad de vitoria porque

si usted como dijo en comisión es favorable a la estrategia de crónicos

porque sencillamente no planificar el ladrillo es condenar para el futuro la atención de las personas no planificar estancias hospitalarias

centro de día urgencias consultas especializadas para la atención de crónicos es sencillamente privar privar a los pacientes de la necesaria solución así que si usted

piense en los crónicos y deje de pensar en otras cosas y desde ya diseñe qué plan tiene para los pacientes de euskadi y en concreto los de vitoria dónde va a atender la demanda creciente de servicios

le aseguro que voy a intentar dejar mejor que la que he recibido jamás hubiera pensado

en los hospitales actuales cuando lo han puesto ustedes porque en las camas en el hospital en la osi bidasoa las han puesto ustedes es la primera vez que oigo a alguien que está haciendo un discurso cien días después de estar el gobierno que parece que hace treinta años que no ha pasado por él

vitoria gasteiz sin camas de subagudos después de que llevan ustedes gobernando

pues no se preocupe que lo arreglaremos no se preocupe que lo arreglaremos me voy a volver a repetir partiendo de la situación actual

pero no la tengo pues no me queda más remedio que utilizar el hospital de leza que por cierto

y bien y no tenga usted duda de que el personal que está en el hospital de leza

y la instalación es muy buena su problema es estrictamente accesibilidad en distancia luego no desmerezcamos ni al personal

no lo merecen prestan un excelente servicio segundo estamos estudiando

en su estructura para dar solución a los crónicos

para dar solución a todos que tampoco eso ha quedado solucionado y tercero yo le he planteado que a corto plazo a corto plazo es posible que podamos necesitar concertar alguna cama para subagudos y no se nos caerán los anillos pero seguimos pensando que nuestro modelo

público y de calidad eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señorías señora consejera

bien nada me satisfaría más que hacer esta pregunta y enseguida felicitar al gobierno hoy o en futuro inmediato

informaciones de distintos medios de comunicación bueno ya contrastadas informaciones eran cuando redactamos la pregunta pero bueno ya sabemos que la

puerto de bilbao adjudicó por trece millónes de euros la terminal logística

la cosa tiene muy mala pinta para los intereses alaveses y para los intereses vascos puesto que pancorbo provincia de se presentaba como el lugar donde el puerto de bilbao había decidido construir

vemos y conocemos que en el país vasco existen infraestructuras logísticas y de transporte perfectamente capaces de asumir una labor de estas características y sin embargo

por adjudicar fuera de nuestra comunidad autónoma el trabajo que el puerto de bilbao necesita para sus operaciones portuarias el gobierno anterior no pudo no supo no quiso defender el hecho de que fuera euskadi

puede haber causado un grave problema a nuestros intereses económicos y de transporte y logística que usted nos deberá explicar o deberá valorar

diputación pues el tema está ahí que la preocupación ha sido así ha habido contactos con el gobierno vasco

sino felicitar hoy pues felicitar próximamente al gobierno en relación con

la situación creada por la decisión del puerto de bilbao de adjudicar fuera de la comunidad autónoma vasca la instalación

como bien ha dicho usted señor barrio la decisión de establecer la terminal ferroportuaria del puerto de bilbao en el municipio burgalés de pancorbo fue adoptada por

portuaria de bilbao en el año dos mil doce a día de hoy

se encuentran elaborando un plan estratégico de la entidad en cuyo proceso se procederá entre otros aspectos a la revisión de la planificación y estrategia comercial del puerto de bilbao priorizando en todo caso a través de los recursos provenientes de su plan de inversiones aquellas participaciones logísticas que puedan aportar significativos tráficos con origen o destina a través del puerto de bilbao

el país vasco se sitúa dentro de la red de transporte de la unión europea transeuropea por lo que resulta imprescindible activar políticas con el objetivo de disponer de infraestructuras logísticas que atiendan la necesidad del transporte de mercancías nuestra comunidad como usted apuntaba

con una red de infraestructuras de transporte ampliamente desarrollada a la que viene a añadirse la nueva red ferroviaria vasca que con su carácter mixto

la configuración del sistema global de transportes las instituciones del país vasco han llevado a cabo

por potenciar el sistema de transportes de mercancías mediante la implantación de centros logísticos multimodales que hagan incrementar la funcionalidad del sistema a partir de la interconectividad a día de hoy es voluntad de este gobierno vasco que euskadi desarrolle su potencial para convertirse en un nodo logístico para el transporte internacional de mercancías y ya que hablamos en concreto del puerto de bilbao

estamos empeñados en impulsar la variante sur ferroviaria y una red de plataformas logísticas ya construidas dentro de nuestro territorio entre las que se encuentran jundiz

y arasur dentro del territorio de álava eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea jarraian barrio jaunak dauka hitza

gracias señora presidenta sí me alegra señora

nos ha llevado a hacer esta pregunta yo creo que álava tiene las condiciones ideales en este momento

de bilbao lamentablemente no solamente la autoridad portuaria anterior sino el gobierno vasco anterior por increíble que parezca

la opción alavesa de la terminal logística ferro portuaria en álava no lo hizo

con solvencia no es que no lo hizo y en ese sentido sí le pedimos a este gobierno que desde luego trabaje en esa opción hemos

hemos pensado también en solicitar la presencia en comisión en el parlamento

presidente de la autoridad portuaria de bilbao asier atutxa

probablemente haremos porque hemos considerado que sus manifestaciones o sus declaraciones de algo

que puede haber una rectificación que puede haber una reconsideración y que en ese sentido la opción alavesa está ahí sigue firme

a la consideración de la cuestión actual en relación con que fuera de euskadi se haga ese puerto seco algunos recursos presentados por empresas que quieren declarar ilegal de alguna manera el proceso de adjudicación ese análisis que

le diré señor barrio que este gobierno vasco se moja se implica y además ya lo ha hecho hemos

con el ministerio de fomento y hemos manifestado

nuestra entera colaboración y disposición para obtener la más amplia optimización de estas plataformas logísticas en particular de las plataformas

de arasur porque como decía antes entendemos que la pieza multimodal que generan estas plataformas junto con el aeropuerto de foronda y junto con el puerto de bilbao son una pieza fundamental recientemente participamos en una conferencia sectorial en la que la ministra pastor nos invitó a

de las comunidades autónomas en esta materia de plataformas logísticas y ya está enviada por escrito nuestro planteamiento con esta apuesta que usted me pregunta eskerrik asko

eguerdi on usted se ha estrenado en su consejería al menos mediáticamente de una manera que convendrá conmigo que ha sido por lo menos

y en especial a una infraestructura que para los guipuzcoanos supone un reto y supone una oportunidad en concreto en relación

y más en concreto aún con la pasante ferroviaria que pretendía y que pretende unir

la pregunta que yo le hago es si es faraónica o si es faraónica porque es en gipuzkoa y en cualquier caso si usted va a utilizar su consejería

contra obras faraónicas esa paralización qué supondrá

yo por puntualizar nunca he hablado de la paralización del metro de donostialdea a lo sumo he mencionado este término para referirme a las obras de la pasante lugaritz la concha

el proyecto completo que se denomina en ocasiones como metro de donostialdea

supone una inversión estimada de setecientos doce coma dos millónes de euros la obras incluidas en este presupuesto son muy dispersas en cuanto costo

hasta ciento ochenta y cinco millónes euros la variante de lugaritz hasta

variada la situación en la que se encuentra estas obras algunas están avanzadas otras

otras actuaciones están en estudio de alternativas etcétera también

hasta la zona de irún y hondarribi también aparecen otras actuaciones como una

etcétera en la legislatura dos mil cinco dos mil nueve se iniciaron las obras de desdoblamiento nuevos trazados y estaciones del conocido como topo

el tramo del nuevo trazado loiola herrera con las nuevas estaciones de

actuaciones todas ellas que están contribuyendo a la mejora de los servicios de transporte ferroviario

en estos momentos se está abordando la última fase del tramo loiola herrera con la estación de loiola

por tanto estamos implicados y aplicados en la

de donostialdea en conclusión no paralizamos el metro de donostialdea el metro que es sobre todo el desdoblamiento y la mejora de la línea métrica en gipuzkoa ya está en muchos tramos en servicio y en ejecución solo hemos parado de momento

aunque seguiremos trabajando codo con codo con todas las instituciones hasta conseguir la solución que cuente con consenso y tenga plenamente reconocida su rentabilidad económica y social

gracias señora consejera pero es que usted convendrá conmigo

metro topo y concretamente la pasante ferroviaria lugaritz easo no es

vaya al buen pastor usted convendrá conmigo

destinada a los donostiarras que es una parte de la infraestructura que da sentido

que conecta en este caso la capital de gipuzkoa con otros municipios del territorio que es una red que es una parte de la red que da sentido por ejemplo

utiliza el topo de irún a donostia lo puede hacer de una manera mejor más moderna más rápida más confortable

lasarte donostia pasando por zarautz por añorga por oiarzun por rentería que los barrios altos de donostia accedan al centro es decir la pasante ferroviaria

de transporte público ferroviario coherente moderna y ágil para gipuzkoa por tanto usted también convendrá con nosotros que no es un capricho

este tramo de la infraestructura a parte de no ser un tramo menor no es un capricho pero claro ustedes y cuando digo ustedes me refiero al partido en el que usted no sé si milita pero desde luego el partido que sustenta al gobierno en que usted está para ser más precisos

siempre hacia gipuzkoa que somos los hermanos pobres de euskadi y claro

en el tramo hondarribia donostia es fundamental porque vertebra euskadi mire señora consejera esto no es el metro de nueva york

esto es bilbao hay equilibrio territorial en cuanto a infraestructuras eso también me gustaría saber usted cree que hay un equilibrio

en este caso del transporte ferroviario nosotros creemos que no cuánto nos va a costar señora consejera la paralización de esta obra cuánto

nos gustaría saber cuánto dinero nos va a costar a los vascos porque la semana que viene van a firmar ustedes un convenio con la diputación foral de bizkaia para garantizar el mantenimiento de las obras de la línea tres

por qué si no hay un equilibrio territorial en cuanto a infraestructuras por qué no corregimos eso si es que no es una cuestión

ya le dije antes también pero tengo que volver a repetir que lamentablemente estos trazados no cuentan con consenso institucional y político y

es más a pesar de existir un acuerdo suscrito por la diputación de gipuzkoa y el entonces consejero señor arriola para la planificación y financiación conjunta del metro de donostialdea

usted ya conoce en qué circunstancias se adjudicaron las obras parciales de estos tramos cuyos proyectos constructivos han sido concluidos con posterioridad a la adjudicación de estas obras

faltaban las autorizaciones de costas etcétera y no teníamos la financiación necesaria para garantizar la continuidad y finalización de las obras hasta su puesta en servicio por tanto

de estas obras en concreto de la pasante qué consecuencias tiene la paralización de los tramos mugaritz la concha la concha morlans

que podremos continuar con la mejora del conjunto de la red de euskotren priorizando las obras con más rentabilidad social y económica disponiendo para ello de los créditos necesarios y además nos permitirá abrir un espacio de trabajo con las administraciones afectadas ayuntamientos y diputación foral de gipuzkoa para lograr la necesaria concertación

señora consejera la legislación más o menos ya me la sabía más o menos

hoy en día el marco regulador de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas establece pero nuestra pregunta era viendo esa legislación usted considera que una estrategia energética que contiene actuaciones

de causar impacto medioambiental como es la explotación de hidrocarburos por medio de la técnica del fracking o el establecimiento de parques eólicos en zonas ambientalmente sensibles si una estrategia de esas características debería de haber tenido una evaluación estratégica es decir en el inicio de la planificación de esas actuaciones se debe incluir la variable medioambiental en este caso no lo tiene no la ha tenido mi opinión y nuestra opinión es que debería de haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental estratégica y no es solamente nuestra opinión es también la opinión por ejemplo que en su recomendación ochenta y cuatro barra dos mil doce establece expresamente para ello recomendamos que el gobierno vasco a través de su departamento de industria

para incluir una adecuada evaluación ambiental de la exploración y explotación de los yacimientos de gas natural localizados en el país vasco por lo tanto creo que está bastante claro y espero porque aquí podemos tener

es cierto que podemos escaparnos por el ámbito formal y decir que esta estrategia

en una normativa de carácter general pero cuando hablamos

hay que tener en cuenta que estamos hablando de la protección del medio ambiente de una estrategia que contiene actuaciones susceptibles de causar daño medioambiental y que por lo tanto

la variable medioambiental supone ejercer el derecho o que las personas puedan ejercer el derecho a un disfrute de un medioambiente

oregi andreak dauka hitza bai he hecho referencia a la legislación a la normativa porque es la que se ha aplicado
pero bueno en septiembre del dos mil nueve se dirigió al órgano ambiental consulta sobre el posible sometimiento del documento al procedimiento de evaluación de planes y programas indicándose conforme al informe jurídico elaborado al efecto que el mismo

sometido a dicho procedimiento no obstante desde el departamento de medioambiente desde el órgano ambiental se sugirió la elaboración de un estudio de evaluación ambiental y a dichos efectos se remitió un documento de referencia a los

sectores consumidores entidades financieras agentes económicos sociales grupos ecologistas centros tecnológicos universidades y asociaciones empresariales se elaboró el estudio de evaluación ambiental

dos mil veinte del veintiséis de julio de dos mil once se sometió a la valoración de este órgano ambiental

informe de evaluación ambiental respecto a los citados documentos en el que se señaló expresamente que la valoración ambiental global de la estrategia energética de euskadi dos mil veinte

y que están a su disposición en el expediente besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda agortuta